le voy a comenzar explicando una cosa señora consejera yo estoy sentado en ese escaño

los guipuzcoanos y es a los guipuzcoanos a los que me debo y pertenezco que se llama partido popular de euskadi partido popular vasco lo que usted tenga que decirle al gobierno de españa

le sugiero o le rogaría a efectos por practicidad por evitarle a usted esfuerzos innecesarios que se lo diga a ellos

elegido los guipuzcoanos y hoy este vienes estoy aquí en una sesión de control al gobierno vasco

y usted tiene una responsabilidad en algo muy importante muy importante y es por su papel como representante del gobierno vasco de mi gobierno porque a usted le interpelo

y es verdad que el mundo puede estar dibujado y coloreado de maneras preciosas y bonitas

confesándole una cosa señora consejera con respecto a la actitud que hemos tenido

precisamente porque creíamos que la crítica precisamente porque creímos en un momento que la crítica podía perjudicar

al desarrollo de este proyecto no la hicimos hace mucho más tiempo y usted lo sabe precisamente porque creímos que denunciando que oponiéndonos que resaltando la incapacidad de gestión de quienes tenían la responsabilidad técnica y política

en este caso precisamente porque creíamos que denunciando eso podíamos perjudicar el desarrollo del proyecto no lo hicimos

créame que no tengo del todo claro que acertara no tengo del todo claro que acertáramos

extrema se lo confieso y yo no estoy mirando al pasado porque me quiera regodear en é lo que creo que es necesario que hagamos una autocrítica

cruda honesta porque es la única manera que podemos tener para afrontar ese futuro del que usted habla que compartimos los objetivos

y que este proyecto está manoseado manoseado políticamente desde luego es una realidad y no precisamente

ni por nosotros y es importante decirlo que este proyecto está pilotado de una manera

manifiestamente mejorable en el aspecto técnico desde que hay un cambio en el gobierno de la diputación y el ayuntamiento de san sebastián es una realidad también como una casa y tenemos que decirlo yo creo que es bueno que lo digamos y es bueno que lo compartamos porque le aseguro que yo no voy a ser corresponsable de este desastre

pero también o fundamentalmente lo tiene que hacer usted porque tiene una responsabilidad que está sentada en ese patronato y más allá de que me diga de que hay una dirección técnica transitoria que ya lo sé y que me diga palabras perdóneme como se lo digo vacías

lo que quiero es la mejor dirección general posible estamos buscando a los mejores para que dirijan este proyecto o estamos buscando otros perfiles

los mejores de europa a mí me gustaría que estuvieran pilotando este proyecto

pero necesitamos a los mejores y hay otros que no quieren buscar a los mejores y quieren que respondan a determinados perfiles y estamos con la cantinela de siempre en este país y esa es una realidad también que conviene no olvidarla y usted hablaba sabe cuánto tiempo han dado máximo para encontrar un director general en esa transitoriedad seis meses dicen transitoriedad

expresado hasta seis meses pero esto es una broma seis meses más

como mucho y seguimos dándole vueltas señora consejera y ustedes llegaron a un acuerdo al que por cierto solo hubo un miembro

y es el nombramiento de la directora general a cambio de la directora cultural y de aquellos polvos señora consejera esos lodos yo le pido un poco de autocrítica un poco que lo exprese y lo comparta y sobre todo qué va hacer a partir de mañana para que esto sea una realidad
y no semejante pesadilla gracias eskerrik asko sémper jauna erantzuteko

porque ya empieza a aburrirnos el llegamos a un acuerdo no es cierto lo hemos explicado

no lo entiendan es decir cómo se ha ido conformando el equipo el año pasado en este último año

una y otra vez por lo tanto no nos vuelvan a decir que esto es un acuerdo porque no es cierto así de claro una persona entra por concurso

todos los miembros del patronato estuvieron presentes y todo el mundo puso si quería podía poner propuestas y salió una

eso para dejarlo bien clarito que ya está bien de decir mentiras una y otra vez para que quede bien en prensa

seguimos autocrítica por supuesto que hacemos autocrítica y reconocemos los errores pero también décimos

vaya resultado no vamos a empezar si empezamos a escarbar por detrás podemos llegar a cosas que no nos va a gustar a más de una persona por lo tanto

qué queremos construir positivamente nosotros creemos en el proyecto

representa también al resto del país vasco y yo también puedo tener mi sentimiento pero también represento a todo el país vasco y es a lo que nos corresponde

por supuesto que nos preocupa el proyecto porque pensamos que es un proyecto que tiene que salir adelante

nos hemos encargado y estamos trabajando los resultados igual no han sido los esperados

pero queremos seguir adelante los seis meses que dice usted de periodo transitorio bueno es una propuesta hasta la idea es que en menos de tres esté solucionado pero en función de cuál sea la vía por la que se opte para elegir al nuevo director general

como se desee buscamos al mejor por supuesto que buscamos al mejor pero no un cualquier mejor también tiene que cumplir una serie de condiciones que se adapten al propio proyecto porque sino

que no sea el proyecto de capitalidad cultural donostia dos mil dieciséis para nosotros resulta apremiante diseñar una estrategia de comunicación que es otra de las cosas que también ha faltado no se ha comunicado el proyecto y como hemos dicho que sea capaz de ilusionar a la ciudadanía y a todo el tejido cultural

que permita dar respuesta a la necesidad imperiosa de socialización de proyecto entonces con

para reconducir la situación y conseguir que la capitalidad alcance el éxito que merece en primer lugar

y social y para ello resulta necesario lograr un pacto social y político y desde aquí invito a todo el mundo a participar en ese pacto social y político

solo a través de una imagen de unidad entre instituciones partidos políticos y agentes sociales

por supuesto que estamos nosotros en el patronato para vigilar e impulsar pero también hace falta el acuerdo de los demás porque sino no vamos a ningún sitio si no tenemos un pacto social si hay otros que se dedican a bombardear el proyecto

pedagógica con respecto al proyecto explicar qué es el proyecto cuáles son los valores cuáles son los aspectos fundamentales y los beneficios que nos van a reportar es muy fácil de esas filtraciones de trocitos del proyecto que digamos qué es esto no no sabemos no esperemos traer un proyecto y ese es el tercer punto presentar y explicar el programa cultural

que lo comprenden pronto se darán a conocer esperemos que sea pronto las actividades que se van a llevar a cabo conjuntamente con la ciudadanía y va a explicar uno a uno las características de cada uno de los proyectos tratando con ello de llegar a las personas atraerlas a proyecto

esta es la vía la vía de la comunicación la participación y el consenso eskerrik asko uriarte andrea

gracias presidenta lehendakari consejeras consejeros buenos días

son cuatro las ocasiones en las que hemos tratado en el pleno de la cámara vasca el tema de san sebastián como capital europea de la cultura dos mil dieciséis y en esta última ocasión porque las dimisiones de la directora general de la fundación donostia dos mil dieciséis así como el de la directora de comunicación y el cese de la directora cultural han hecha tambalear los débiles cimientos de este proyecto estratégico en una cruda

este proyecto de cultura para la convivencia estamos ante el mayor cúmulo de despropósitos que los donostiarras hemos conocido en veinticinco años en la gestión de un proyecto estratégico de ciudad de territorio

y en el que están implicadas las instituciones en todos sus niveles incluso en el europeo y nos decía la consejera de educación el pasado mes de febrero y cito literalmente que el gobierno vasco trabaja conforme a las recomendaciones de la comisión de control y asesoramiento de las capitales europeas de la cultura

de los asuntos institucionales para que puedan concentrarse

en la organización del excelente programa artístico que es lo que permitió ganar la candidatura y nos decía también la consejera que se había trabajado duro para conformar un equipo técnico capaz de reconducir de manera satisfactoria

y que desde el gobierno vasco animaban y apoyaban a este equipo en su trascendental labor para desarrollar y gestionar el mejor proyecto pues bien señora consejera algo no se habrá hecho bien cuando con toda crudeza nos estalla

dos mil dieciséis en un espectáculo lamentable y vergonzoso que se está dando ante toda la ciudadanía

desde hace dos años y medio venimos asistiendo a una perversa ecuación capitalidad europea de la cultura san sebastián dos mil dieciséis igual a mala noticia o en su variante igual a conflicto interno y las señales de alarma son evidentes y nos indican que la ejecución del proyecto de san sebastián dos mil dieciséis

y a su rigor están en serio peligro han transcurrido treinta meses desde la elección de san sebastián como una candidatura ganadora de la capitalidad europea de la cultura y este evento declarado por las instituciones como estratégico e histórico se ha preparado de forma

a la vida cultural de la ciudad de forma totalmente ajena a la ciudadanía

sometido su desarrollo a conflictos internos continuos y qué ha ocurrido para llegar a esta situación cuáles son las claves de esta deriva pues bien para los socialistas son las siguientes una falta absoluta de liderazgo para impulsar el proyecto

abierto con motivo de la presentación de la candidatura faltan ideas con la que alimentar la ilusión colectiva en el periodo previo a la llegada del dos mil dieciséis con actividades culturales en torno a ese eje está el grave y continuo problema de coordinación interna de un equipo técnico

está un presupuesto muy limitado por ausencia de gestiones para conseguir patrocinios privados

y hay una acción sectaria por parte de bildu que con la conformidad también del gobierno vasco al menos con su complicidad ha ido eliminando al equipo anterior

anterior de la candidatura y estas claves y la absoluta desconexión con el trabajo de preparación de la candidatura y con la red de relaciones tejidas en la fase anterior

hasta el espectáculo esperpéntico de estos días pasados y al que los socialistas vascos como mucha ciudadanía en general hemos asistido dolidos

y lo he dicho ya en tres ocasiones anteriores en esta tribuna en esta misma tribuna

para que este proyecto estratégico saliera adelante para que la capitalidad europea de la cultura san sebastián dos mil dieciséis tuviese éxito al menos estuviese en la senda del éxito

y el proyecto está en crisis porque en crisis están también estos tres ámbitos de actuación no hay liderazgo

en este proyecto no hay un solo patrocinio privado al día de hoy

hoy están en calma chicha en la ciudad no se respira capitalidad europea de la cultura y la ciudadanía que es lo peor y lo más grave no se siente para nada implicada pero más allá de estas críticas y asumiendo la realidad y la gravedad de los hechos los socialistas creemos que tenemos una obligación

y por eso hemos hecho llegar a los representantes de las instituciones en la fundación donostia san sebastián dos mil dieciséis una serie de propuestas y aportaciones para que sean contrastadas y de este modo poder contribuir a recuperar ese tiempo perdido y la credibilidad de un proyecto cultural europeo llamado san sebastián dos mil dieciséis nuestras aportaciones

sino que además culmine que sumen a las que ustedes puedan proponer y por eso entre algunas acciones le comento algunas reponer las piezas básicas del equipo técnico nombrando en la dirección general en la dirección cultural y en la gerencia

del programa que se presentó en el proyecto de la cultura para la convivencia olas de energía que nunca debieron perder ni su papel ni su liderazgo

le proponemos también crear un consejo cultural de participación con representación de las más importantes entidades organizaciones y colectivos así como empresas del ámbito cultural

y del conjunto de gipuzkoa de euskadi y de españa para que funcione como un espacio abierto de encuentro consulta contraste e implicación colectiva

crear una red de embajadores y embajadoras de donostia san sebastián dos mil dieciséis amigos y amigas de esa capitalidad a nivel nacional e internacional

apoyen difundan prestigien y abran puertas a la fundación y al equipo del comité ejecutivo definir una política de comunicación que vuelva a ilusionar a la ciudadanía y al tejido cultural del país vasco

desde la transparencia el rigor y la profesionalidad proponemos recuperar la relación con la red de ciudades europeas y españolas

además de utilizar las herramientas de difusión cultural que tiene el ministerio de cultura

hemos visto lo ocurrido hemos mostrado nuestra voluntad a reflotar este barco encallado es grave la situación y queremos saber señora consejera qué propósitos qué acciones concretas

eskerrik asko presidente andrea señora corcuera tal y como he mencionado en mi primera intervención

asumir la realidad de la situación así como reconocer los errores cometidos es decir aquí estamos haciendo un ejercicio de autocrítica

en todo caso tampoco podemos olvidar ni obviar que no fueron precisamente

a formar parte del patronato donostia dos mil dieciséis porque si bien ahora nos quieren hacer ver que existía un elevado grado de consenso y una estabilidad total del proyecto

no estuvo exenta de inestabilidad e inoperancia de hecho le recuerdo

con nuestra incorporación al patronato cuando el ministerio de cultura comenzó a tomar parte activa en el proyecto cosa que no se consiguió mientras estaban ustedes en el gobierno

como ahora nos lo quieren hacer ver pero esta no ha sido la única dificultad que hemos tenido

la inestabilidad y el continuo bloqueo que sufría el equipo directivo fue

quizás no era todo ni tan fácil ni tan bonito como nos lo quieren pintar sin embargo

palabras como amateurismo inoperancia y politización que han inundado los diarios ensuciando de este modo la imagen de la capitalidad

ha citado si tal vez y eso digo tal vez porque nunca sabemos si ustedes si hubieran encargado de cumplir la necesaria labor de vigilancia para la creación de un equipo sólido y consensuado antes de que llegáramos nosotros al gobierno

con garantías de éxito tal vez no hubiéramos llegado a esta situación

cuando llegamos tuvimos que asegurar la inversión requerida para garantizar la estabilidad económica del proyecto ya que anteriormente no se había hecho una previsión económica al respecto

y en segundo lugar nos hemos visto obligados a reformular el equipo directivo si bien este segundo aspecto no resultó sencillo

y esto es lo primero que se nos solicitó cuando nos incorporamos en el patronato que había que renovar el equipo directivo y parte de ese equipo directivo se

otra parte viene de cuando está bildu y los socialistas están en el gobierno y esta es la última fase en la que estamos que tan pero claro nadie se acuerda de lo anterior porque también hay un antes en el que nosotros no estábamos y aquí nadie dice nada parece que aquello fue una maravilla

en todo caso como he dicho en mi anterior intervención no son momentos de reproches no podemos quedarnos mirando atrás tenemos que avanzar

hiriburutza ikusi eta usaindu egin behar da donostiako plaza eta txoko guztietan para ello se deben dejar de lado los personalismos

y recalco las tres personalismos afanes de protagonismo y reproches conviene recordar que este no es un proyecto de un partido ni de una institución

una capitalidad europea de la cultura que se nos presenta como una ventana abierta al mundo una oportunidad que no podemos perder sería un fracaso un fracaso colectivo del que no estamos dispuestos a participar

se debe retomar el liderazgo como bien ha comentado colectivamente y abordar la recuperación de la credibilidad y la ilusión hacia el proyecto cultural usted ha planteado una serie de aportaciones como le dije a la persona que a mí me las ha enviado por lo menos le diré que cualquier cosa que sea buena para el proyecto

eso no quiere decir que vayamos a cumplir cada una de ellas porque todo necesita su acuerdo pero desde luego todas las aportaciones que sean en beneficio del proyecto son bienvenidas y así

y desde luego lo que sí pensamos es que ahora más que nunca necesitamos estar unidos sumar avanzar y crear energía positiva

pero todo esto tiene que ser desde el consenso y el acuerdo institucional político sobre todo político y social que resulta imprescindible para garantizar la necesaria estabilidad del proyecto

abogamos por un pacto social y político que dé respuesta a todas las personas que creen y confíen en el proyecto un pacto que integre a los diferentes sectores sociales culturales económicos como puede ser las universidades artistas empresarios con independencia de ideologías colores y creencias un pacto acorde a la filosofía integradora del proyecto

experiencia en redes de trabajo en los proyectos estratégicos de donostia dos mil dieciséis

consejera tiene un serio problema con el término autocrítica igual tendría que ver también usted la culpa que puede tener el partido nacionalista vasco en que bildu esté al frente de la diputación foral de gipuzkoa y del ayuntamiento de san sebastián yo espero que sus propósitos

de protagonismos de un exceso de protagonismo sabe cuándo acaban los protagonismos cuando hay un verdadero liderazgo

malas notas que usted comentaba yo espero de verdad consejera que sus propósitos

usted ha contado aquí sirvan para que el proyecto cultural de capitalidad europea san sebastián dos mil dieciséis retome la senda que nunca debió abandonar insisto consejera

vascos a colaborar con propuestas que suman con aportaciones de buena fe que hemos trasladado a la fundación a todos los miembros de la fundación

se pueda contribuir a nuestras posibilidades de desarrollar un exitoso

un exitoso proyecto mire cuando los socialistas vascos participamos en la elaboración de la candidatura a la capitalidad europea de la cultura nos implicamos hasta las trancas por qué porque el proyecto nos apasionó señora consejera pero no nos apropiamos de él lo compartimos

y con toda la ciudadanía que quiso formar parte de él con todos y de ahí surgió la ilusión colectiva y las olas de energía ciudadana de ahí los socialistas no inventamos nada

y la ciudadanía sabe qué paso que respondió hoy ese no es el caso hoy en donosti no se respira capitalidad europea de la cultura y estamos a un año y ocho meses de que este evento comience y lo que es peor es que comienza en dos mil dieciséis pero no se agota en el dos mil dieciséis y el problema es que hoy

y por lo tanto está casi agotado desde el inicio ese es el problema esa es la acción que le estamos pidiendo y este es un proyecto estratégico e histórico

pero también es un proyecto de futuro para el territorio y para euskadi y por eso no se puede trabajar en él con una visión estrecha con una visión localista con una estrategia partidista ni con un afán sectario

ocurriendo los miembros de la fundación san sebastián dos mil dieciséis tienen que tener el proyecto de cultura para la convivencia en la cabeza día sí y día también semana tras semana mes tras mes

y ocho meses que quedan para ese evento para que se inicie el dos mil dieciséis no podemos echar a perder consejera ni lehendakari esta oportunidad histórica para donosti para toda euskadi

un instrumento de cambio de transformación social

a un gran reto y es el de aprender a vivir juntos gentes diferentes esa es la esencia de ese proyecto por el que apostamos los socialistas en su momento

el reto de aprender a vivir juntos gentes diferentes y por eso le pido consejera y también al lehendakari implicación acción

en este proyecto san sebastián dos mil dieciséis porque fue apasionante y porque el reto merece la pena y le pido consejera

realista en ello nos va mucho gracias eskerrik asko corcuera andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den uriarte andreak

podríamos pasar horas y horas analizando el pasado repasando sucesos haciendo recuento de aciertos y errores pero insisto

de nada sirve mirar hacia atrás debemos salir reforzados de esta situación

impulso al proyecto deseamos que lo sucedido haya sido un punto de inflexión como he dicho tenemos año y medio por delante pero no cometamos el error de desperdiciar el tiempo restante en continuar por la senda de la crítica y del descrédito nuestra apuesta es clara y contundente

quisiera finalizar mi intervención tendiéndole la mano a usted y al partido que usted hoy representa somos conscientes de que estuvieron allí en el inicio de este proyecto

ilusionaron a la ciudadanía y queremos hacerles partícipes también en esta fase que resulta crucial para su culminación

usted misma ha descrito en alguna ocasión este proyecto como el proyecto estratégico más importante que tiene san sebastián para un momento en el que se pretende iniciar la salida de una crisis

social y de participación ciudadana que estamos dispuestos a lanzar a favor de este proyecto conseguiremos a través del necesario pacto social y político que la capitalidad donostia san sebastián
alcance el éxito que se merece eskerrik asko uriarte andrea

señora presidenta señoras y señores parlamentarios lehendakari consejeros y consejeras buenos días

secretario general de paz y convivencia del gobierno vasco presentó las conclusiones de un sociómetro en relación con diversas cuestiones

la actitud del gobierno español y alaba la actitud del gobierno vasco señor lehendakari hemos alucinado con esta encuesta de qué sirve de qué sirve esta encuesta es decir si hay que encontrar

hay que acercar posturas hay que buscar puntos de encuentro de qué sirve arremeter de esta manera gratuita confrontar

del mencionado socio metro solicitamos su respuesta qué criterio queremos saber el criterio de verdad ha movido al gobierno vasco a realizar una

en lo relativo a asuntos que parecía que se debían mover en la discreción y en el acercamiento como planteó el señor jonan fernández al inicio y usted también

cómo valora los criterios con qué criterio se ha hecho esa encuesta sondeo en relación con esa cuestión

yo creo que no ayuda en nada ese tipo de argumentos que son propaganda para la secretaría general de paz y convivencia que no ayudan desde luego a acercar posturas arremeter contra el gobierno de españa les resulta a ustedes muy fácil pero en cualquier caso

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor barrio permítame leer una pregunta

está usted muy de acuerdo bastante de acuerdo bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con la forma en la que el gobierno vasco está afrontando el problema del terrorismo

y con la forma con que el gobierno español está afrontando el tema del terrorismo

es una de las preguntas formuladas en el estudio dos mil quinientos noventa y tres por el cis el centro de investigaciones sociológicas del gobierno español

sabe por qué porque es lógico porque tanto el gobierno vasco como el gobierno español

el gabinete de prospección sociológica del gobierno vasco ha hecho lo mismo que el cis lo mismo que el cis y lo mismo que el euskobarometro

la cuestión relevante señor barrio no es la pregunta sino la respuesta el problema que usted tiene no es el estudio sino que en todos los estudios la sociedad vasca critica la inacción del gobierno español ante el nuevo tiempo hau da benetako arazoa ez alde egin errealitateari

gracias presidenta pues es irresponsable señor lehendakari no nos fiamos

no nos fiamos esta encuesta está hecha para lo siguiente el gobierno de españa lo está haciendo mal o muy mal el gobierno vasco bien o muy bien

acordar con planteamientos de inicio como este es decir preparando el terreno pues para la confrontación

el gobierno vasco bien por encima de todos las peores valoradas eta y peor valorada todavía

que eta el gobierno de españa es decir esto para qué ayuda señor lehendakari a qué nos ayuda todos esto

apoyadas y reconocidas mientras ellas protestan sin parar en relación con determinadas cuestiones luego hablaremos también de esa cuestión y todo para qué esta encuesta para qué señor lehendakari esta encuesta solamente para arremeter para

para arremeter contra el gobierno de españa y eso sí eso sí para que quede una cosa bien clara el lehendakari iñigo urkullu sigue siendo el único líder con aprobado

arremetemos contra el gobierno de españa eso sí el gobierno vasco lo hace bien y el lehendakari es el único que aprueba yo señor lehendakari

sirven para ensuciar para entorpecer relaciones esto es ayudar

en relación con el follón que usted tiene ahora en la secretaría de paz y convivencia y con lo que tiene que construir usted tiene que construir en base a su liderazgo no en base a construcciones

políticas lamentables como en este caso vemos esta encuesta no sirve para nada señor lehendakari eskerrik asko barrio jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu anderea admitido que pueda usted criticar la encuesta del sociómetro vasco

para qué ayuda la pregunta del estudio del cis y admitido que pueda usted cuestionar

atienda usted por lo menos lo que dicen otras encuestas como el euskobarómetro o el deustobarómetro también esas son cuestionables

mire le propongo que no se quede en lo anecdótico y reflexione

los resultados del sociómetro coinciden con los que ofrece el euskobarómetro y más recientemente insisto el de deustobarómetro y qué dice la sociedad vasca cuando se le pregunta

así lo afirma el ochenta y uno por ciento de la población ocho de cada diez personas hay un amplio espacio central de consensos éticos y democráticos en materia de paz y convivencia

afirma que el gobierno español está actuando bien o muy bien hay una valoración crítica sobre la forma en que el gobierno español está gestionando este nuevo tiempo lo paradójico es que la valoración de la actuación del gobierno español ahora en dos mil catorce es mucho peor que la valoración de los años noventa y nueve y dos mil seis cuando ustedes el partido popular también gobernaban

y ahora que nos encontramos más cerca que nunca de la paz y la convivencia es cuando el gobierno español se sitúa más lejos de los que es percepción de los ciudadanos y ciudadanas vascos y vascas

para que el partido popular también cambie de actitud eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako hamahirugarren puntua

zurea da hitza señor consejero señor lehendakari cada uno que se arrogue su cuota de

llegado a un punto de descrédito tal de la política de quienes hacemos política que casi cualquier decisión que en otros momentos podría ser razonable hoy se cuestiona nosotros lo vamos a hacer a nosotros nos parece bien

que los consejeros y los parlamentarios profesionalicemos y mejoremos también

porque cuanto mejor se exprese cuando mejor comunique un consejero o un parlamentario

mejor se va a ejercer la responsabilidad que tenemos encomendada como nos parece muy bien

inglés chino es decir nos parece bien porque al final redunda en el beneficio de los ciudadanos como nos parece bien que los

a pío baroja es decir esto está muy bien pero señor consejero

que esos trabajos sean encomendado a una empresa

con el partido que sustenta al gobierno gracias eskerrik asko sémper jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

pueden derivarse de la misma primero la justificación de los cursos segundo el coste de los mismos y tercero la técnica de adjudicación a cuál de las tres podría referirse usted concretamente porque el señor maneiro

pero usted pertenece a un partido que ha gobernado y gobierna en muchas partes

a cual de las tres cuestiones podría referirse usted a la primera no podía ser porque yo fíjese supe que existían los cursos de la oratoria de la mano de muchos diputados de su grupo parlamentario allí en madrid

y me consta que muchos de ellos han recibido esos cursos y

a veces con cargo al erario público y otras veces con cargo a los costes del partido como usted bien sabe efectivamente estos cursos tienen una determinada cotización en el mercado porque cuando están dirigidos para

o privadas pues tienen un formato obligado en el que los costes son los que son mire con respeto a la adjudicación

la adjudicación he hecho antes una referencia a ella hay una previsión específica en la ley estatal

expresamente contemplada para los supuestos de los contratos menores los contratos menores se adjudican libremente se pueden adjudicar libremente a cualquier empresario

que tenga capacidad de obrar y tenga la habilitación profesional indispensable para prestar los servicios de los que se traten dentro de ese margen

en alguno de los supuestos de incapacidad para contratar que aparecen en la ley la contratación es lícita legítima y absolutamente válida a todos los efectos legales es una contratación menor que no sirve francamente se lo digo

en año y medio de vida que tiene este gobierno escaso todavía

a lo que usted califica de empresa amiga es una miseria con eso no se mantiene una empresa

si en ningún momento he dudado de la legalidad y ni del procedimiento

lo que está en cuestión señor consejero lo que pasa que en política y sabe usted que en estos momentos quienes están en la calle desconfían de nosotros

hacia los partidos políticos a quienes hacemos política y creo que somos precisamente quienes hacemos política

y cuando el gobierno vasco toma decisiones debe de ser también consiente de eso

probablemente la cantidad es usted ha dicho irrisoria sobre todo teniendo en cuenta el contexto de los presupuestos generales de la comunidad autónoma pero hay cosas que en cuanto a formas deberían ser cuidadas porque creo que a todos nos va en ello a mí no me beneficia a nosotros no nos beneficia que ustedes se equivoquen en este tipo de cosas porque yo creo que nos

porque lo primero que hace un ciudadano cuando lee la información y dice cuatro mil ochocientos euros que probablemente para muchos ese dinero sería fantástico para llegar a fin de mes dice ya están otra vez los políticos adjudicando eso entre sus amigos los contratos

les perjudica a ustedes a los consejeros que han recibido los cursos espero y veremos aquí el buen resultado de los mismos

pero nos perjudican a cierta manera a todos y

y me duele profundamente más cuando es en el mío se lo puedo asegurar esto no es un caso de corrupción

querido poner la comparación para decirle que soy de los primeros que está implicado y perjudicado por ese ejercicio pero en este caso concreto para que

tenemos que despejar cualquier gesto de nepotismo ustedes elaboraron y aprobaron

iba a decir un manual que no lo es y perdóneme que se me ha ido el santo al cielo pero un código ético bien hagámoslo extensivo

y de verdad yo creo que un error por su parte haber adjudicado a una empresa amiga

porque no redunda en la confianza necesaria que tenemos que proyectar entre los ciudadanos y cuatro mil ochocientos euros en el contexto de los presupuestos de la comunidad autónoma es verdad que es una cantidad irrisoria

fortuna y que se destine a unos amigos

yo no sé lo que exactamente califica usted de empresa amiga no sé

por un profesional del periodismo que

en el gobierno vasco pero que en la actualidad no los desempeña no sé por qué esa circunstancia le inhabilita para ser adjudicatario de un contrato menor insisto de un contrato menor

directamente no sé de qué manera puede eso perjudicar

quiere usted decir que a partir del momento en el que el pnv accede al gobierno a partir de ese momento están inhabilitadas todas las empresas que tienen a su frente alguna persona

que ha pertenecido o que milite en el partido nacionalista vasco para contratar con el gobierno

estas cantidades insisto con contrataciones menores a los amigos

no se beneficia y esto no es un caso de corruptela en fin no voy a poner ejemplo pero

es que se nos reiría a la cara con contratos menores de verdad no se beneficia a nadie son cuantías irrisorias que no van a ninguna parte eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señor lehendakari creo que falta un gesto relevante y notorio de este gobierno el gobierno vasco hacia las víctimas del terrorismo con esta frase contundente y demostrativa de una determinada actitud ha calificado el recientemente cesado asesor de la secretaría de paz y convivencia del gobierno vasco para las víctimas del terrorismo el señor txema urkijo la posición

para que esta reflexión se haga por parte del asesor de víctimas

algo grave pasa en relación con esta cuestión en el gobierno vasco en relación con esta cuestión la secretaría de paz y convivencia en ese sentido le preguntamos al lehendakari

que le ha llevado a usted a su gobierno a no tener un gesto relevante y notorio con las víctimas del terrorismo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio me pregunta usted por un gesto relevante y notorio con las víctimas del terrorismo

he hecho muchos durante muchos años y por referirme solamente al ámbito parlamentario

o por referirme a personas de otras formaciones políticas también anteriores a esta legislatura el señor huertas o el señor loza del partido socialista de euskadi

que también está ausente en este momento de la cámara del grupo nacionalistas vascos o el señor abascal también anteriormente de su propio partido el partido popular mire he participado en todos los gestos relevantes y notorios que se venían haciendo además

uno relanzamiento del consejo vasco de participación de víctimas del terrorismo dos extensión del programa adi adian de presencia en las víctimas en las aulas consensuado con la comunidad educativa sabe usted y si no lo sabe se lo digo yo he estado reunido con las víctimas educativas con las víctimas educadoras yo

tres primer estudio de opinión de las propias víctimas realizado mediante entrevistas personales cuatro informe sobre la denegación de indemnizaciones a víctimas del terrorismo cinco primer estudio público integral sobre atentados

son cinco nuevos hechos a mi juicio son mucho más que gestos y son desde luego muy irrelevantes no le pido que estemos de acuerdo en todo

anteriores al día de hoy y también en el mismo día de hoy que tenemos un espacio para reflexionar y criticar para debatir y acordar medidas con una visión de medio y largo plazo

de este parlamento retomar este espacio de reflexión crítica de trabajo compartido sería también un gesto
relevante y notorio con las víctimas del terrorismo por su parte señor barrio estoy convencido de ello eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

en materia de víctimas del terrorismo por qué lo dice díganoslo por qué lo ha dicho cuál es ese gesto relevante y notorio que le ha pedido a usted que haga y que no ha hecho

porque se lo habrá dicho se lo habrá dicho mire con actitudes y con reflexiones

el asesor en relación con estas cuestiones conocido por todos y con larga trayectoria en esa cuestión en cuestiones y con reflexiones como esa acusándole al gobierno vasco de que no hay gesto relevante y notorio con la víctima del terrorismo detrás de todo eso no puede ser una reflexión a bote pronto ni mucho menos algo tiene que haber y algo usted no nos cuenta

es que saltan por los aires los compromisos y objetivos del plan de paz y convivencia con esa reflexión que ha hecho el señor urquijo saltan por los aires saltan por los aires la ficha cuatro relativa a las víctimas del terrorismo del apoyo reconocimiento reparación de las víctimas del terrorismo

quien ha estado en las tripas de esa cuestión ahora dice lo que dice esa ficha salta por los aires y salta por los aires los dichosos microacuerdos el microacuerdo el compromiso ético

víctimas en el primer microacuerdo en el segundo microacuerdo el compromiso político

que se olvida del pasado pero qué ha pasado ahí qué ha pasado

de valoración que yo creo que es estética en relación con la cuestión pero algo ha fallado

no nos cuenta en relación con ese planteamiento esa reflexión que se ha hecho por parte del señor asesor

gestor relevante y notorio pensamos que detrás de eso hay algo que usted algún día

pero seguramente que no usted nos ha invitado antes en la

y sin embargo se le descubren usted una vena rara o contradictoria yo creo que está mirando demasiado a ese lado en relación con esas cuestiones se lo hemos dicho muchas veces a la hora de hablar

y la ponencia bueno está como está y desde luego con actitudes o como reflexiones

tiene por ahora yo creo que lo que usted tiene que hacer señor lehendakari es disolver la secretaría

yo creo que tiene que usted asumir el liderazgo yo creo que

señor barrio si busca titulares supongo que ya habrá conseguido el titular con esta última frase que usted ha dicho en la pregunta anterior pero mire

cuando fue asesor no lo dijo y creo que siendo lehendakari le aseguro que yo siendo lehendakari he sido leal

reitero los nuevos hechos señor barrio porque obras son amores

con la verdad el informe de esclarecimiento de atentados así lo demuestra comprometido con la memoria el instituto de memoria va a ser realizado este año comprometido con la justicia y también con la reparación invertimos con convicción en este compromiso social que las víctimas merecen

hemos participado todos los años en el día de la memoria el grupo nacionalistas vascos lo hemos celebrado todos los años también este año pasado aunque en este año pasado en este caso sin su participación señor barrio

sobre las víctimas a quienes dedicamos este día de la memoria su participación en el día de la memoria de dos mil catorce de este año en el que estamos sería todo

su informe de cumplimientos de acuerdos parlamentarios remitido a esta cámara el veintiocho de febrero que dice exactamente

de hecho la norma foral guipuzcoana reguladora del mismo objeto está

y por la abogacía del estado quiero decirle en primer lugar que

esta demanda de pregunta sobre el acuerdo del diecisiete de octubre se inscribe dentro de los muchos debates que hemos tenido en esta cámara

en la contratación pública pero su informe se basa básicamente en estos recursos decirle en primer lugar que el auto de febrero de dos mil catorce el tribunal superior de justicia deniega

que pide la abogacía del estado por lo tanto esta norma sigue vigente y en segundo lugar

de la autoridad vasca de la competencia está soportado por un informe también remitido el diecisiete de diciembre que ha sido plenamente superado por la directiva quince de enero de dos mil catorce relativa a la contratación pública que deroga la directiva dos mil catorce barra dieciocho en la que se funda

le voy a decir básicamente unos considerandos que plantea esta directiva de enero en aras de una integración adecuada de requisitos medioambientales sociales laborales en los procedimientos de licitación pública resulta especialmente importante que los estados miembros y los poderes adjudicadores

aplicables en el lugar en que se realicen las obras se presten los servicios derivadas de leyes reglamentos decretos decisiones tanto nacionales como de la unión así como de convenios colectivos el considerando treinta y nueve dice las respectivas obligaciones podrían reflejarse en cláusulas contractuales también debe de ser posible incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos de conformidad con el derecho de la unión en los contratos públicos el incumplimiento de las respectivas obligaciones podrían considerarse una falta grave

pero como no voy a tener tiempo para ello le voy a decir en el texto articulado lo que dice los principios rectores de la contratación de esta directiva tan reciente los estados miembros tomarán las medidas pertinentes para garantizar

social o laboral establecidas en el derecho de la unión el derecho nacional los convenios colectivos o por las disposiciones de derecho internacional medioambiental etcétera quiero decir existe marco normativo

la sujeción a los convenios colectivos ustedes en la explicación que dan en ese informe plantean que hay serias dudas lo que les digo es que con la más reciente directiva europea ese marco normativo habilita a su gobierno a hacer lo que el mandato parlamentario del diecisiete de octubre

van a cumplir con ese acuerdo parlamentario eskerrik asko itxaso jauna

mire señor gatxagaetxebarria este es un trámite muy breve y yo no puedo dar lectura a todos los considerandos y a las partes articuladas del texto

si lo que usted me quiere decir es que el gobierno se está refugiando en una alambicada interpretación que da como resultado que no que no van a cumplir con ese acuerdo parlamentario

entre los muchos debates que aquí se han planteado sabe también que hay una iniciativa legislativa popular emprendida por una central sindical que plantea todo esto la confederación europea de sindicatos

saludó y celebró la directiva mencionada precisamente porque despejaba cualquier duda sobre el hecho de que se incluyan convenios colectivos de aplicación del lugar en la contratación pública que es lo que pedíamos

es decir si ustedes pretenden enredar esta madeja situándola en una dispersión interpretativa

sí muchas gracias presidenta buenos días señor erkoreka le hablo de la sociedad pública ibarzaharra participada por el gobierno de españa

el gobierno vasco y el ayuntamiento de sestao vean lo que hemos leído en diferentes medios de comunicación en relación a esta empresa

ha ocurrido y por lo que le pedimos aclaraciones veintidos de enero del año dos mil catorce trabajo investiga

sin ir a su puesto de trabajo la inspección de trabajo dependiente del gobierno central

sin ir a trabajar un inspector ha realizado ya diversas actuaciones sobre la actividad laboral de juan cruz nieves quien fue diputado foral vizcaíno de urbanismo y director gerente del consorcio de transportes

treinta de enero de dos mil catorce despedido el ex alto cargo del partido nacionalista vasco que cobra

sin trabajar el ex alto cargo del partido nacionalista vasco que ha cobrado de una empresa pública

este jueves en concreto tres días después de que upyd registrara esta interpelación treinta y uno de enero de dos mil catorce el ex alto cargo del partido nacionalista vasco que cobró doscientos diez mil euros no devuelve el dinero

no le van a exigir devolver el dinero al menos de momento la empresa pública va a esperar al informe de la inspección de trabajo que investiga el caso desde noviembre para ver

trabajo sanciona al ex alto cargo que cobró doscientos diez mil euros sin ir a trabajar

ha confirmado las irregularidades el acta de inspección ha sancionado tanto a juan cruz nieves como a la empresa pública

a nieves le obliga a devolver las cotizaciones a la seguridad social de esos tres años y a la empresa pública le impone una multa por lo que considera una infracción muy grave bi de abril de bi mila hamalau el gobierno el caso nieves en el parlamento vasco puesto que upyd había registrado esta iniciativa son informaciones gravísimas que crean alarma social y que a mí particularmente

yo no sé si esto es así si esto no es así si usted tiene más información de la que dispone upyd

pienso que todo esto debe ser aclarado en fin se dice se rumorea se cuenta que prácticas tan vergonzosas como esta han sido y son habituales ya digo que es algo que a mí

es algo que yo personalmente no puedo creer que pueda ocurrir

y sigue ocurriendo en el presente y desde luego me gustaría que cosas parecidas a estas si es que realmente es así no puedan volver a ocurrir nunca más en euskadi en esta información y efectivamente señor erkoreka yo he leído información

también he leído en información periodística que la entrada de nieves en la sociedad se produjo como fruto de un pacto político en dos mil once entre el partido nacionalista vasco y el partido socialista de euskadi

al ex alto cargo ante lo que iba a ser su inminente jubilación todo esto he leído yo en la prensa durante las últimas semanas también he leído que el informe de la inspección

pero no hay ninguna actuación porque al haber transcurrido más de cuatro años queda prescrito se trata de otro destacado miembro del partido nacionalista vasco el ex director de radio euskadi y del diario deia íñigo camino que cobraba cincuenta y ocho mil euros brutos anuales durante la etapa en que estuvo en el puesto

a septiembre de dos mil nueve en fin

creo que merece una explicación y es lo que nosotros le pedimos cómo explica esto

qué se puede hacer qué se va a hacer gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

notable a su interpelación no previamente avisada porque hoy ha reproducido usted una interpelación que efectivamente formuló hace dos semanas y después retiró

pero que no se centraba en las irregularidades

su pregunta se centraba en interpelar al gobierno por si tenía previsto dar parte o trasladar todas estas cuestiones a la comisión de ética del gobierno vasco y este es el sentido por el que la respuesta en principio me correspondía a mí dentro de la labor o el reparto de funciones entre los consejeros que integramos el gabinete

en la que la participación del gobierno es minoritaria alcanza un veintidós coma cinco por ciento es por tanto una sociedad participada pero con una participación minoritaria del gobierno vasco había anunciado una comparecencia en comisión monográfica sobre esta cuestión de la consejera del ramo de la consejera de la que depende spri y por tanto la participación en esta sociedad de la que usted habla una comparecencia que no tuvo lugar porque quien la solicitó

le corresponde a la consejera del ramo yo no quisiera invadir su terreno

aquí a dar respuesta a la interpelación tal y como usted la había formulado hace un par de semanas que hoy

formuló bien por lo que se refiere a la pregunta que usted plantea en concreto a lo que interesa propiamente en su

el hecho de que usted se refiera al código ético

mire este código ético el que rige la actuación de los altos cargos y equivalentes y equiparados del gobierno vasco

pero sí es el primero que se cita con normalidad en el debate político parlamentario e incluso mediático lo que pone de manifiesto que es

de credibilidad los demás se tuvieron más por estéticos

y tiene sentido porque este código ético efectivamente contempla mecanismos de seguimiento y de evaluación contempla la existencia de una comisión inédita en el estado español participada por miembros relevantes del exterior ajenos a la propia administración pública que actúa que revisa

que resuelve todo tipo de consultas y de denuncias que se puedan formular y que de hecho viene actuando ya

hay un código ético que funciona y una comisión ética que gestiona el código ético y que lo aplica

motivo de satisfacción creo yo hay catorce resoluciones que dictó esta comisión ética durante el año dos mil trece y en lo que llevamos de dos mil catorce otras cuatro resoluciones digo a instancias normalmente de los propios interesados para formular consultas o para hacer denuncias

hay un referente ético positivo constructivo en la política vasca que está

para muchos debates políticos parlamentarios e incluso mediáticos porque se cita con una profusión

otro dato que sí quisiera llamar la atención en relación con este asunto lo de los códigos éticos y las comisiones éticas para su seguimiento no es algo privativo de los ejecutivos

si usted tiene ocasión de repasar lo que ha este respecto dice el informe

del grupo europeo de países contra la corrupción constituido en el seno del consejo europeo el informe remitido

porque se refiere concretamente a la lucha contra la corrupción en españa se refiere en concreto a las medidas que a su juicio

deberían adoptarse en la adjudicatura española en la fiscalía española y en los parlamentos españoles se refiere básicamente a las cortes generales y no a los parlamentos autonómicos pero lo que vale para las cortes generales podría servir también para los parlamentos autonómicos en la medida que se encuentre en la misma situación y ahí propone expresamente literalmente

que se recomienda para el congreso y para el senado la creación de códigos de conducta expresos que permitan enjuiciar la actuación de los propios parlamentarios desde el punto de vista ético con

hecho llevado a cabo por parte de organizaciones participadas por representantes exteriores no solamente por comisiones integradas por los propios parlamentarios que siempre tendrían a operar con un criterio más laxo a la hora de ponderar

si es propósito del gobierno trasladar esta cuestión

creada por este gobierno el veintiocho de mayo del año dos mil trece

no es una especie de fiscalía universal que desarrolla investigación ilimitadas para perseguir posibles vulneraciones del código ético actúa en instancia de parte

lo ha hecho en catorce ocasiones durante el dos mil trece y en cuatro en lo que llevamos del año dos mil catorce

en cualquier caso actúa a instancia de parte en segundo lugar en este caso a quien correspondería promover la actuación de la comisión ética sería lógicamente

sectorial competente en la materia que es el más directamente concernido en la correcta o incorrecta gestión que pueda desarrollarse en las empresas participadas por las sociedades dependientes por el propio departamento o adscritas al propio departamento en cualquier caso el código ético

del gobierno vasco solo se aplica a las personas a los cargos y asimilados que aparecen recogidos en su apartado segundo exhaustivamente que empiezan con el lehendakari pasan por los consejeros y termina con los directivos de las empresas públicas siempre que sus órganos se adhieran voluntariamente

un proceso de adhesión voluntaria al que se sumaron trescientos veintisiete personas

que desempeñan responsabilidades en el gobierno o en el sector público vinculado al mismo

directivos o asimilados de empresas públicas sociedades fundaciones públicas o cualquier otro de los tipos de organismos que se articulan

del gobierno claro en ningún caso se contempla la adhesión al código por parte de directivos de empresas participadas por el gobierno y con participación minoritaria

al que usted se refiere no está incluido en el ámbito de aplicación del código ni se adhirieron los directivos de la empresa

al código de conducta porque no se trata de una empresa pública del gobierno el gobierno tiene una participación minoritaria en el mismo ni tampoco sé

a la gerencia es propiamente un cargo directivo habría que ver exactamente cómo está configurado ese cargo en los estatutos de la propia sociedad para ver cuáles son sus funciones y si puede ser o no caracterizado

como directivo por lo que se refiere a las conductas que usted me describe porque dice que los ha leído en la prensa

pues no son muy constructivas pero yo sobre eso no puedo hacer valoraciones

ninguna valoración porque creo que eso corresponde en su caso a la comparecencia monográfica que sobre este particular está anunciada ya próximamente y es

la sociedad cuáles son las mayorías en la misma cuáles son

y cuál es la composición o ha sido la composición del consejo de administración cuando se hicieron los nombramientos de esas personas y se garantizó el seguimiento de su comportamiento durante el tiempo en el que estuvieron vinculadas a la sociedad todo esto

en esa comparecencia monográfica muchas gracias eskerrik asko erkoreka jauna maneiro jauna zurea da hitza

señor erkoreka usted no hace valoraciones sobre estos hechos que han sido perfectamente explicados en la prensa y que yo le he planteado a través de esta interpelación usted no tiene nada que decir en relación a esto el gobierno vasco no es responsable de lo que ha ocurrido en esa empresa pública el gobierno vasco participa en esa empresa pública

o ustedes no sabían nada si usted no puede responder evidentemente tendrá que ser la consejera la que en turno de réplica no sé si el reglamento lo permita

esto que nosotros pensamos que es un absoluto escándalo y usted ha pasado la mayor parte del tiempo filosofando sobre la cuestión pero sin entrar en el asunto concreto que yo le he planteado

y de las personas del partido nacionalista vasco que han cobrado sin ir a trabajar un escándalo no sé si esto es habitual en

puede que sea habitual porque efectivamente lo hemos denunciado durante largos años

como agencias de colocación de determinados partidos políticos para colocar

bastantes pero en todo caso yo lo que pido al gobierno es una aclaración una aclaración porque debe saber el gobierno vasco qué es lo que ha ocurrido ahí dentro y en concreto yo le quiero preguntar cuál ha sido la actividad de la empresa durante los últimos años

quiero preguntarle si ustedes consideran que es necesario que exista la figura de gerente adjunto para este tipo de empresas

el hecho de que dos personas del partido nacionalista vasco hayan sido nombradas gerentes adjuntos en los últimos tiempos exijo que se nos aclare el hecho de que no hayan ido a trabajar y sin embargo hayan cobrado que nos aclare el hecho de que la inspección de trabajo de bizkaia

las irregularidades el hecho de que ni el gerente de la empresa ni el gobierno de españa ni el gobierno vasco ni la diputación foral de bizkaia ni el ayuntamiento de sestao

ni hayan denunciado que el gerente adjunto no iba a trabajar me imagino que habrá que recuperar ese dinero por cierto cuántas personas más

y cobrando un sueldo ese dato lo conocen ustedes nos lo pueden aclarar lo cierto es que llueve sobre mojado ya digo casos similares se han dado en el pasado ha habido episodios similares ahí está

es posible es probable que existan otros casos similares ahora mismo en la actualidad es un hecho

muchas de las empresas públicas alguna de las empresas públicas utilizadas como agencias de colocación para que determinados partidos políticos coloquen ahí a sus partidarios y esto nos parece absolutamente bochornoso la propia inspección de trabajo ha confirmado las irregularidades personas del partido nacionalista vasco colocadas ahí que no iban a trabajar y sin embargo cobraban un sueldo señor erkoreka usted tiene que dar explicaciones sobre la cuestión

pero tiene que decir algo sobre la cuestión no puede decir que la interpelación planteaba en otros términos este asunto porque nosotros hemos venido a hablar aquí de la empresa ibarzaharra

amigos del partido nacionalista vasco que según se ha publicado han venido cobrando un sueldo sin ir a trabajar es un escándalo si usted no puede responder a esto que lo haga la consejera tapia que está sentada a su derecha pero que lo haga ahora

que aquella comparecencia tres horas antes fuera desconvocada por razones que también desconocemos

moción para que se aclare todo esto porque nos parece realmente absolutamente bochornoso eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko

que usted ha reorientado su interpelación no hay ninguna duda si quiere repasamos exactamente en qué términos está formulada su interpelación de la semana pasada

en la que concreta su petición a partir de ahí bueno yo no tengo ningún inconveniente para hablar del fondo del asunto lo que no quería es que usted me reprochara a mí que no estoy contestando a lo que usted concretamente plantea

hechos que usted ha citadoes lo siguiente efectivamente estamos hablando de una sociedad pública en la que el cincuenta por ciento corresponde sepi infoinvest estado el

y el ayuntamiento de sestao el cinco por ciento restante lo que significa que la composición del consejo de administración es de la siguiente manera cinco miembros la mayoría

la mitad al gobierno central dos miembrosal gobierno vasco dos

usted ha hecho referencia el del señor camino como adjunto a la gerencia el uno de abril del dos mil ocho

de los diez miembros del consejo de administración están designados por administraciones ocupadas por el partido socialista el cincuenta y cinco por ciento

el setenta y siete coma cinco por ciento del consejo de administración ocho de sus diez miembros son del partido socialista designados por administraciones en manos de partido socialista y su presidente era nada menos que josé luis marcos merino

que no le imagino haciendo favores gratuitos al partido nacionalista vasco

usted comenta no sé si estos datos se corresponden o no con lo que dice usted que figura en la prensa pero esto es el dato real también hay otro dato real que es preciso conocer

dos mil once el letrado de ibarzaharra designado por el estado

en manos del partido socialista decía literalmente en relación con el asunto que plantea usted la estructura de personal de la compañía funciona con normalidad

le dice la estructura de personal de la compañía funciona con normalidad particularmente el adjunto

continúa desarrollando funciones que recoge su relación personal con la compañía no requiriendo las mismas presencia física en las oficinas

del letrado designado por la representación del gobierno central en manos del partido socialista obrero español no acabo de ver la connivencia que usted sugiere

tampoco está en manos del partido nacionalista vasco estaban en manos

entre el partido que ahora está en el gobierno y la existencia de unos de sus militantes en la plantilla de una sociedad pública en la que la influencia de este mismo partido el partido nacionalista vasco era

de los diez miembros del consejo de administración es que no acabo de ver como no estemos hablando de un contubernio general en judeomasónico entre nacionalistas y socialistas si está sugiriendo usted algo de esto a lo mejor tendría que acreditarlo de manera más fehaciente

es que durante todo este periodo las mayorías en esa sociedad las tenían representantes de administraciones en manos del partido socialista

ocho miembros en representación del partido socialista de los diez integrantes del mismo

qué favores iban a hacer a un militante del partido nacionalista vasco

y la actuación está acreditada certificada en esta lectura que acabo de hacerle del informe del letrado de la administración central en el seno del consejo de administración

ahí sí que me gana muchísimo de hecho su fuente de inspiración es la prensa básicamente para sus iniciativas parlamentarias es el parlamentarismo a impulsos de titulares

por supuesto de que el gobierno en próximos requerimientos pueda abundar y profundizar más en la información que tiene a su disposición pero que la clave es esta

sobre las actuaciones que debe realizar el gobierno vasco para dar esperanza a los

desempleados de euskadi y el lehendakari no le contestó a las preguntas concretas sobre el cumplimiento de las promesas que hizo en dos mil trece para crear empleo porque no puede

es la adecuada el lehendakari especialmente está estos días dando datos de evaluación económica

porque se nos induce a pensar que ya estamos bien y no es cierto es verdad que parece que apunta a la salida de la recesión pero antes de ayer el presidente del elkarri decía que la situación es textual

aún es muy pequeñito que la demanda interna no repunta que aún existen muchas incertidumbres y que no se puede asegurar que estemos ante una salida sostenible

y en cualquier caso en euskadi en lo fundamental que es el empleo empeoramos en vez de mejorar la realidad consejera es que en euskadi se sigue destruyendo tejido industrial en enero de este año había menos empresas

y en febrero menos que en febrero de dos mil trece estamos peor que hace quince meses

mejoran algo pero las empresas no ven todavía que aumenten

como para contratar alguien y esto es letal porque la industria es lo que genera riqueza que a su vez fomenta el consumo la actividad económica

algún empresario me ha dicho que será verdad que hay luz al final del túnel pero que no sabemos a qué distancia está

como un puntito por resumir la situación le diré que como consecuencia de la crisis de nuestras empresas el paro está creciendo

que el desempleo juvenil está descontrolado el consumo privado estancado los salarios pierden poder adquisitivo pero la productividad la buena la que no se basa en la rebaja

el crédito a las empresas está por debajo de lo que sería necesario y la desigualdad

también en euskadi también en nuestra sociedad aunque estemos en términos relativos mejor que el resto de españa total estamos peor que cuando empezó la legislatura la economía está hecha polvo y ustedes consejera el gobierno hoy es mi pregunta qué han hecho desde que llegaron hace ya quince meses para afrontar el aumento del número de empresas

no hablo de planes llenos de descripciones sino de actividades concretas creo que ha habido poco como le he dicho en alguna otra ocasión en su actuación hay mucha consultoría y poca política industrial mucho divorcio entre lo que dicen

que es importante y lo que hacen por ir citando algunos casos relevantes que son importantes para afrontar la crisis de nuestras empresas

creo que estamos de acuerdo estoy seguro que estamos de acuerdo porque lo hemos hablado

por su importancia para producir que un valor añadido alto porque sino no podremos competir y la única forma de asegurar el futuro de salir fuertes de la crisis

sin embargo en dos mil trece su gobierno dedicó a esas convocatorias catorce coma siete millónes de euros

y en dos mil catorce veintiuno coma siete millónes menos que en dos mil doce lo que supone casi un catorce por ciento de disminución en un momento de crisis vital para nuestras empresas disminuyen

y de las universidades son proyectos que se aplican directamente en la producción

y lo ha eliminado pero es que además y esto sí es muy grave

ustedes gestionando mal estas ayudas además de recudirlas están mal gestionadas y le digo por qué

de las ayudas concedidas en dos mil doce que tenían que haber pagado en el primer trimestre de dos mil trece un año de retraso y no sé cuánto más

lo que está concedido a finales del dos mil doce la pregunta es qué va a pasar con las ayudas de dos mil trece tal como van

a ese retraso se une también el retraso en la concesión de las ayudas

entre el treinta y uno de enero y el veinticinco de febrero de este año nunca había ocurrido no se trata solo del perjuicio de un retraso son convocatorias de encuadre

con lo cual lo que incentivador y se da cuenta usted también del perjuicio para nuestras pymes con esta tardanza en la resolución

afecta a su funcionamiento también por eso hoy sí quiero transmitir mensaje invertir más y gestionar mejor en este asunto

rememos juntos que unamos los esfuerzos de todos los agentes implicados

a la concertación social al diálogo social y sigue su gobierno

a todos aquellos agentes que quieran trabajar juntos por sacar a nuestras empresas de la crisis crear por lo tanto empleo crear riqueza y esto es un deber inexcusable de un gobernante el lehendakari tiene que cumplir su papel de liderar el diálogo social que ayude

no cambiar los focos del acuerdo o no hablar con una parte en privado y con otra todo lo que haga estará bien no

con la finalidad de salir adelante de la crisis y lo demás es dejar que pase el toro

porque me quedan unos cuantos elementos más sino sigo en la réplica para luchar contra la crisis de nuestras empresas pero decir que la sequía de crédito sigue siendo cierta cuando se anuncia que los bancos van a aumentar el crédito eso

bancos como santander bancos privados van a dar créditos cuando las empresas estén en unas condiciones

imprescindible por ejemplo cuando una empresa es viable pero tiene problemas de balance para reestructurar su situación es bueno un crédito participativo una toma de participación del gobierno tenemos el fondo que tiene por ejemplo esa virtualidad pero resulta que ese fondo en dos mil trece solo invirtió la tercera parte de lo que había invertido en dos mil doce en la pasada legislatura

en la participación de las entidades de previsión social voluntaria que anunció el propio lehendakari

con mucha para luego quedarse en nada al final

pero actuaciones no muy allá en cuanto al emprendimiento que es una salida en tiempos de crisis al menos para las personas que se quedan sin trabajo están en sus planteamientos que hacen públicos confundiendo muchas veces el emprendimiento de oportunidad con el de necesidad el autoempleo que tiene más que ver con las políticas de empleo

no han aplicado consejera una herramienta fundamental el desarrollo de la ley de apoyo a los emprendedores ni la han tocado no han desarrollado nada cuando es obligación desarrollarla ampliamente tampoco han utilizado el programa

puesto en marcha la pasada legislatura y que lleva un año muerto un programa potentísimo en la red que estaba siendo muy utilizado y que

de dos mil trece y luego nada seco

están basando sus mensajes en separar la marca

la cantidad de dinero que nuestras empresas obtienen del icex

lo favorable que son las sinergias entre nuestra actividad exterior y la del icex para lograr un mayor rendimiento para nuestras empresas sabe usted perfectamente que lo que obtienen de los fondos del icex nuestrasempresas va más allá

ha comentado bastantes cosas además de las que aparecía en la interpelación pero trataré de responder tal como usted me interpelaba a todo lo que me dice

y tener una capacidad de desarrollo importante

un instrumento que coadyuva a prever que nuestras empresas se encuentren en situación de crisis nos han tocado tiempos difíciles efectivamente

van muy lentos y los países en crecimiento también van más lento de lo que esperábamos

tras veinte años de crecimiento nos encontramos en una situación muy compleja tras veinte años en los que nos ha permitido dotarnos de unas cotas de bienestar importantes

hemos destruido empleo y todavía seguimos destruyendo empleo está claro

no hay todavía creación neta de empleo a pesar de que se van creado empleos todavía las personas que demandan empleo son más sin embargo los datos

han mejorado y están por primera vez en índices positivos desde hace bastantes años a corto plazo no esperamos que el contexto económico de euskadi mejore en exceso se prevé un crecimiento moderado con una recuperación muy progresiva

muy lenta y donde todavía el consumo interno también es

no se lo niego estoy completamente de acuerdo todavía es de gran incertidumbre y todavía de un crecimiento muy lento para ello aparte de tomar decisiones concretas

en el que nuestras empresas pasan dificultades atraviesan dificultades y dificultades importantes pero lo diseñamos para precisamente recuperar y recuperarnos

creciente y de forma sostenida para el futuro el plan contempla distintas medidas que combinan ayudas a la recuperación a empresas en dificultades y ayudas a otras empresas que se encuentran en una situación adecuada pero que tienen que preparase para el futuro

al desequilibrio entre costes empresariales productividad restricción de crédito con la que evidentemente estamos de acuerdo que existe no podemos negarla

y la ausencia de financiación desde luego están lastrando nuestra economía de una forma muy intensa la vía que están buscando nuestras empresas muchas de ellas para hacer frente a esto es precisamente la internacionalización en la que

y estamos completamente de acuerdo que todas tienen que bogar y tienen que remar juntas todas las herramientas que existen en todos los niveles de la administración

presente de forma competitiva en el mundo internacional todas las medidas son adecuadas nuestro plan de internacionalización empresarial es

de poner medidas ad hoc a sus necesidades a aquellas que todavía no han empezado a salir al exterior

en el nivel de exportación pero sin implantación y ese es nuestro reto y trabajar de forma conjunta con todas y cada una de las administraciones poniendo en valor nuestras capacidades por supuesto

la marca de euskadi es un valor importante pero voy a ir a algunos datos en relación con esos aspectos industriales y financieros de los que me hablaba en el ejercicio dos mil trece se suscribió un convenio de colaboración un convenio de financiación con las sociedades de garantía recíproca usted me hablaba del programa que anunciaba el lehendakari con las epsv

para facilitar financiación a nuestras empresas financiación de circulante para nuestras pymes hasta la fecha este programa ha apoyado ochocientos doce operaciones y se han financiado con ciento veintisiete millónes de euros además

y se han formalizado un total de cuatrocientos cincuenta y ocho operaciones por un importe de ochenta millónes de euros en conjunto por tanto con las sociedades de garantía recíproca

además se ha mantenido en vigor el convenio de financiación suscrito en la legislatura anterior con entidades financieras

por un importe total de ciento veintiuno millónes de euros en total son por tanto

de ayuda a financiación de circulante de nuestras pymes con entidades financieras y se han aprobado en un total de trescientos veintiocho millónes de euros no es suficiente

para la financiación de circulante pero en este caso vinculado a pedidos o contratos extraordinarios que pudieran tener nuestras empresas y que tuvieran riesgo de perderse por escasez o ausencia de financiación en los dos últimos ejercicios se han concedido en total veintiséis coma dos millónes de euros a esto deberíamos añadir otros instrumentos ya existentes como los fondos de capital riesgo los convenios ordinarios de funcionamiento con luzaro

todas ellas son herramientas importantes al servicio de pymes y orientadas a paliar de alguna forma las consecuencias de la escasez de financiación

evidentemente hemos puesto en marcha las operaciones no todas las que nos hubieran gustado sino aquellas que podemos soportar

no es por falta de financiación es por falta quizá de capacidad suficiente de nuestras empresas para que puedan acompañarnos en la entrada en capital usted bien sabe que cuando entra el capital este necesita un acompañamiento de igual forma de las empresas y en ocasiones no tienen

en emprendimiento me extraña que me lo comente porque usted bien sabe que el próximo martes

del desarrollo de la ley de emprendimiento traemos a esta cámara para su debate el plan de emprendimiento y tenemos una sesión de la comisión correspondiente donde podremos hablar

de acuerdo y en colaboración con las tres diputaciones forales por tanto un plan interinstitucional pero entrando en el tema concreto de las empresas en crisis

la comisión europea es absolutamente restrictiva como usted bien conoce en cuanto a las ayudas públicas que se pueden dar a una empresa en crisis cuando aquellas hubieran perdido el cincuenta por ciento de sus recursos propios

o el veinticinco por ciento en el último ejercicio sabe que en esos casos las instituciones públicas

no obstante ante la grave situación en la que nos encontramos hemos conseguido obtener la autorización de la comisión europea para la puesta en marcha de un programa que ya funcionó hasta el año dos mil nueve

para poder trabajar abordar procesos de reestructuración y relanzamiento de empresas que se encuentren en una viabilidad un tanto compleja en un determinado momento por tanto hemos puesto en marcha todas las medidas a nuestra disposición

a la crisis y no me gustaría terminar este primer turno sin hacer referencia a algo que no figuraba en su interpelación pero sí tengo un dato y es el referido

y solamente le voy a leer un dato la comunidad autónoma de euskadi sigue manteniéndose muy cerca del grupo de países con alta innovación en relación al dos mil trece

con el grupo de líderes en innovación y como usted bien dice nuestros programas nuestras herramientas son incentivadoras y ayudadoras realmente los que invierten son nuestras empresas y se está observando que están invirtiendo y para finalizar el programa saiotek precisamente al que acuden los organismos intermedios de innovación nuestras empresas no utilizan ese programa utilizan los programas

no utilizan en su mayoría ese programa no es el más importante utilizan de forma muy minoritaria nuestras empresas utilizan otros programas por tanto aún así

que se han sacado de dos mil trece siguen siendo realmente positivos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

sí presidenta consejera yo dice que hay algún elemento que no estaba

acabadas o iniciadas anteriormente y usted me está hablando del futuro

yo le estoy hablando de quince meses de legislatura porque nos preocupa

de eso le estoy hablando le he puesto datos del dos mil trece y de los tres primeros meses del dos mil catorce todos los datos se referían a eso

de crisis de empresas y por lo tanto con un paro que aumenta sin parar una con evolución peor que el resto de españa de eso estamos hablando y no es cierto

que estemos cerca que estos datos van a evolucionar favorablemente pronto tardará la recuperación del empleo tardará y no se sabe cuánto y el ritmo además de crecimiento ligerísimo

amortizar el desempleo que tenemos para crear empleo y usted lo sabe en cualquier caso por remitirnos siempre

los datos cerca hoy mismo se publican unas declaraciones del sector de máquina herramienta emblemático para nosotros acaban

por ciento y el incremento que tuvieron en el dos mil trece se correspondía en su mayor parte con contrataciones hechas en el dos mil doce porque sabe que tienen

los datos son esos en cuanto a los planes voy a hacer una primera respuesta general

va siendo hora de que situemos un poco esto

los portavoces y las portavoces de distintos grupos

que está constantemente anunciando planes que va a hacer planes presenta el borrador

llevamos quince meses si es que esta sociedad no es una sociedad

maravillosamente ahora en todas las familias sin problemas de empleo con pleno empleo

que van a aprobar planes para actuaciones futuras muchísimas la mayoría no son de este año y lo veremos cuando discutamos plan a plan

quiera vender que hace cosas que se mueve que no se está quieta pero

va bien o mal porque va no por la actuación del gobierno porque fíjese que a emplazamientos concretos de datos no me ha dicho lo que ha hecho durante estos quince meses

lo que pretende hacer que ya lo discutiremos mire circula un chiste y es verdad

y tecnología dos personas en dos sitios distintos me lo han comentado y es que comparan estos planes que está sacando

en el cual con piezas todas iguales de distintos colores haciéndolas girar se hacían composiciones distintas pero siempre eran los mismos elementos con los que se jugaban claro son gente despierta los de la red ya saben y entonces ellos dicen que sus planes son iguales

los mezcla les da vueltas y tal y al final son siempre los mismos programas movidos de una forma o de otra cambia el color cambia lo otro el plan lo mismo y además añado yo

que ha dicho usted antes son los programas que había

es difícil y fíjese yo no critico ni siquiera eso

lo que critico es que se pase quince meses encargando consultorías para jugar como el cubo de rubick y que saque un producto con los elementos que ya teníamos por ejemplo en la financiación

son los elementos que habido siempre solo que con menos dinero con menos financiación nada más todo lo que me ha dicho y fíjese en la pasada legislatura en el dos mil doce ya el gobierno aplicó

en dos mil doce ahora se está empleando menos y

cargado discutiremos los planes que vienen y cada uno en su momento y sí quiero decirle que también la gestión de los problemas es muy criticable

le he dado datos si usted no me ha querido escuchar no me ha querido escuchar datos concretos datos concretos de financiación de situación de como está el índice de producción industrial no he hablado del ine he hablado del índice de producción industrial que no me lo invento yo que son datos estadísticos

y en este momento se encuentran en valores positivos cosa que no habían estado desde hacía bastantes años

vamos a ir a los datos y vamos a ser coherentes con lo que estamos hablando me habla de que el plan de emprendimiento no lo hemos traído hasta ahora claro porque había que trabajarlo es que no

y el anterior ejecutivo no trajo el plan de emprendimiento como consecuencia de la ley lo hemos trabajado con las tres diputaciones forales y lo tenemos ahora

al hilo de lo que aparece en el plan de emprendimiento me habla de que no hay nuevas herramientas

se está trabajando y otra cosa es que usted no lo quiera ver me habla

maquina herramienta evidentemente en la previsión que se hace en este momento fruto de la situación es la que es la han hecho ellos yo no la voy a discutir evidentemente me dice que en el dos mil trece

uno muy importante por cierto que consiguió subir esos niveles hacía finales de año y no voy a hablar de la empresa concreta pero los hay en dos mil doce y dos mil trece

ellos también hablaban de otro aspecto y es que en la próxima feria de máquina de herramienta precisamente la tendencia que se observa

y número de empresas interesadas crece un doce por ciento por tanto hay

negativos y otros algo positivos y eso es precisamente la situación todavía de incertidumbre en la que nos estamos moviendo pero si décimos lo negativo digamos lo positivo para que no

apoyada con el gobierno luego hay iniciativas concretas que si usted no las quiere ver pues es usted muy libre en cuanto a los chistes que

ahora bien con la red vasca de ciencia y tecnología se está haciendo un trabajo muy serio dejando al borde las bromas con mucha implicación por su parte por cierto se lo agradezco aprovechando está tribuna

y ustedes verán los resultados para hacer una red mucho más eficiente y mejor y no es precisamente ni un cubo de rubik ni nada similar y no lo dirán en ese sentido porque desde luego es una modificación profunda de su forma de funcionamiento

de verdad se está trabajando mucho y bien y lo están trabajando de forma muy callada muy discreta y a la vez muy intensa y a los

estadísticas realizadas con metodologías europeas y bien contrastadas y bien definidas dicen que en dos mil trece nuestra red vasca de ciencia tecnología e innovación sigue soportando a nuestras empresas que son las que de verdad invierten y las que de verdad

colaborador ayudador fomentador e incentivador es nuestro trabajo no se preocupe usted que el departamento de hacienda que preside el

de cómo se da cuenta de la ejecución de esos programas y cómo se da cuenta a la comisión europea y cómo se da cuenta

a toda la fiscalización europea cuando viene por tanto no se preocupe usted por eso porque ese seguimiento se hace de forma exhaustiva como siempre se ha hecho por otra parte porque hay

estupendo de ello por tanto vamos a remitirnos a los hechos a todos por favor gracias eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako

en la nota de prensa enviada por los responsables

se anuncia para este año dos mil catorce un déficit superior al previsto en el plan de viabilidad a pesar de eso

fía usted el cumplimiento del equilibrio operativo en dos mil dieciséis a que aumenten los ingresos y disminuyan los gastos tanto

por ciento esa es la condición para que se cumpla lo que prometen y fía además ese aumento de ingresos a una futura recuperación económica que eleve la demanda magnífico el equilibrio operativo a dos años que han vendido públicamente con mucha seriedad resulta que está en función de que la economía se recupere o no

será una broma o no consejera porque una construcción

que asciende ya a seiscientos veinticinco millónes de euros y que estamos pagando aún

que además está sobredimensionada y que funciona con unas pérdidas que cubrimos también

ahora resulta que los mismos que son responsables de la situación nos dicen que dejará de tener pérdidas de funcionamiento si la economía mejora y si no

que ya los resultados obtenidos en el ejercicio dos mil trece han sido bastante peores que los que tenían presupuestados la facturación por ejemplo

el año pasado la facturación bajó en dos coma ocho millónes de euros y las pérdidas de explotación han sido de cinco coma ocho millónes y a pesar de datos tan concluyentes sigue manteniendo usted que el bec alcanzará el equilibrio operativo

diciendo de alguna forma que en ningún caso estamos trastocando la previsión para el dos mil dieciséis creemos que podemos llegar y ese es el objetivo que nos hemos planteado pero evidentemente

como todas las actividades otra cosa es el coste de la construcción de todas formas cuando estamos hablando de resultados de evitas vamos

uno los evitas contemplados en el plan de competitividad y sostenibilidad a cinco años los evitas resultantes los reales que existen en cada año y los contemplados en el presupuesto son tres cosas distintas y evidentemente como en cualquier empresa no siempre coinciden porque excepto en el gobierno y en una institución pública en la que evidentemente todo tiene que estar ajustado

siempre van a ocurrir imprevistos y las previsiones no suelen ser exactamente igual que los resultados de todas formas

lo hemos aprobado y lo vamos a llevar a cabo otra cosa es que tiene que estar ligado a la actividad económica por supuesto pero las previsiones que contemplamos en este momento son de que llegamos a esa expectativa de mantenimiento del equilibrio económico en el año dos mil dieciséis

el resultado será de un uno coma dos y usted sabe que los resultados son peores en el dos mil trece que los previstos porque además tenemos que hacer frente a

sí consejera el problema es que todas las empresas

al que hay que hacer un plan de choque porque es insostenible la situación no basta decir que ganaré un poquito más un poco menos o creemos que vamos a llegar a un equilibrio la cosa va mucho más allá

tienen que cubrir por una parte cada año el déficit de funcionamiento y por otra

que vence en dos mil veintisiete y de otro de ciento cincuenta millónes que debería empezar a pagarse ahora y como los pésimos resultados de gestión hacen imposible la devolución de estos prestamos con recursos propios las administraciones tendrán que aportar cada una este año

de euros las administraciones la diputación foral de bizkaia y el gobierno vasco de los impuestos si se refinancia el crédito de ciento cincuenta millónes en este caso espero que nos diga cuántos millónes más nos costará eso debería usted explicar

porque este plan de competitividad no sirve mire en este plan yo me lo he estudiado

para llegar pero no dice en ningún caso cuantificando cómo va a llegar a ello lo dejan a ver si suena la flauta o no

y eso para una infraestructura de esta envergadura que está sobredimensionada y que está financiado con dinero público no es

reprocharle que hace menos de un mes usted dijo que se cumpliría

el equilibrio en el dos mil dieciséis y no me respondió a la pregunta del déficit cuando yo lo sabía

había sido en diciembre y nosotros nos hemos reunido hace escasamente un mes

que concrete no como un deseo cómo va a llegar a cumplir el equilibrio financiero
y cuál es el futuro qué plan prevé eskerrik asko reyes jauna

señor reyes el plan de choque el plan de sostenibilidad existe

detalladamente con todos y cada uno de los ejes y cómo se estaba cumpliendo todos y cada uno de los ejes ese plan existe y lo estamos cumpliendo por cierto

en el que se tienen que celebrar ferias y evidentemente la principal actividad

del director general y de todas las administraciones que estamos ahí es conseguir el máximo número de ferias porque es lo que hace

nos dé resultados positivos en cuanto a la refinanciación de la deuda que tenemos en este momento también lo comenté en aquel momento lo repito para junio de dos mil catorce se habrá terminado la refinanciación y evidentemente no tenga usted ninguna duda que pasaremos todos los datos a todos los grupos de esta cámara para saber

se ha refinanciado y cuánto más va a suponer para cada una de las administraciones eskerrik asko

de todo lo que se pueda comentar y de todos los aspectos negativos que se puedan encontrar como en cualquier sector el apoyo institucional ha sido vital para conseguir que nuestro sector primario esté en el lugar que se encuentra en estos momentos

un ascenso importante y donde a pesar de todas las crisis a partir de dos mil once en plena crisis nos encontramos en situación de superávit beraz

gure eredu honekin gainera gertatu dira hainbat gauza se han recuperado ciertas producciones actividades que habían desaparecido como la del aceite se han regenerado y se han reorientado otras existentes

que para ser un modelo viejo y tan caduco como usted hace referencia creo que se ha demostrado que funciona
y que sigue funcionando bien y ahí vamos a continuar eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

egun on la clave del concepto de ayuda de emergencia social es precisamente la necesidad perentoria y urgente de atender una situación de carencia o estrechez de recursos económicos que se produce en un momento dado

que cada vez están sufriendo más familias las ayudas de emergencia social constituyen un recurso paliativo son prestaciones económicas que esperan recibir

y extraordinario y que previenen y palian situaciones de exclusión social

el alquiler de una vivienda para pagar gastos derivados de intereses de amortización de créditos para gastos de energía agua basura alcantarillado y también para gastos relativos a las necesidades primarias no cubiertas con otras ayudas como son el vestido la educación formación y atención sanitaria entre otras hoy más que nunca cobran sentido las ayudas de emergencia social

no debe obviar que cada vez son más las personas las familias que acuden a los ayuntamientos a solicitarlas el año pasado recibieron las ayudas de emergencia social

la orden anual reguladora de las aes para este año dos mil catorce se aprobó

y se publica hoy en el boletín oficial del país vasco

para cada uno de los gastos específicos contemplados en las ayudas de emergencia social y señala los criterios para la distribución de los créditos consignados para su cobertura y fija el límite presupuestario que corresponde a cada uno de los ayuntamientos vascos señor consejero este año la orden se ha aprobado más tarde que nunca

la orden se aprobó conjuntamente con el decreto cuatro barra dos mil once

la orden del dos mil doce se aprobó en diciembre del dos mil once la orden reguladora de las ayudas de emergencia del dos mil trece se aprobó en marzo de ese año

corresponde a los ayuntamientos tramitar las ayudas de emergencia social y desde primeros de enero están dando citas y recepcionando las solicitudes

porque a día de hoy ninguno de los doscientos cincuenta y dos ayuntamientos vascos han recibido aún la transferencia de crédito que les corresponde por las ayudas de emergencia social señor consejero de estas ayudas penden muchas familias que no entienden como en plena crisis económica un gobierno que dice situar a las personas en el centro de sus políticas que dice tener compromiso con las personas haya retrasado hasta el mes de abril la aprobación de la orden anual de las aes esto no parece

cuándo prevé el gobierno vasco que efectuará la transferencia de crédito a los ayuntamientos vascos correspondiente a las cantidades consignadas en los presupuestos generales de la comunidad autónoma vasca para las ayudas de emergencia social de dos mil catorce

sí señor consejero le agradecería que me complete la información que me concrete con más detalle cuándo

y no olvide que las ayudas de emergencia social contribuyen a paliar situaciones de pobreza y exclusión social de muchas personas que sufren las consecuencias

a más personas a más familias de nuestra comunidad autónoma eskerrik asko sarasua andrea erantzuteko gatzagaetxebarria jauna zurea da hitza